no ha sido posible en este punto llegar a un acuerdo con el grupo proponente pero sí que es verdad que compartíamos mucho de lo que venía en esa propuesta y también mucho de lo que

ha explicado ahora rebeka ubera en el atril y tampoco con los partidos que sustentan el gobierno

altua da entre otros problemas laborales además tenemos que mencionar la precariedad la congelación salarial

la no recuperación de los complementos de it la no reducción de horas lectivas

sustituciones y hablando de interinidad llegamos a la gestión de las ope llegamos a ese dato preocupante de más del treinta y tres por ciento de interinidad

por la falta de planificación de la renovación en la plantilla en los últimos años que va a suponer que tengamos

dos mil veinte que se vayan a jubilar más de cuatro mil personas y unos cientos más inmediatamente después y que sigamos sin un plan de este gobierno

a la vuelta de la esquina durante los años dos mil trece y dos mil catorce no se convocaron ope en el año dos mil quince

años en los que por otra parte también el gobierno de españa el partido popular prohíbe

público pero es que nos ponemos a hablar ahora de la gestión de la ope

la cena del día siguiente se envía por parte del gobierno a la representación sindical una primera información

información con ya una propuesta de ochocientos dieciocho plazas de primaria secundaria

se envía una definitiva entiendo el día ocho de enero

yo creo que casi señaladas son indicativo de algo si lo son en mi opinión en nuestra opinión

y de falta de planificación lo son de desdén hacia la representación sindical del personal de enseñanza y lo son en definitiva el desdén hacia la comunidad educativa del sistema

consideramos que lo que sí sería necesario hacer ya es planificar

que tiene entiendo debería haber un compromiso presupuestario pero pensamos que no solo hay que hablar de la ope de bi mila hemezortzi pensamos que ante esta situación que nos viene

ya al menos el conjunto de la legislatura concretar las ope anuales del conjunto de la legislatura en el documento del pacto de gobierno entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi

en el empleo al profesorado con convocatorias anuales de ope creo que es el momento y por eso no firmamos esa transacción de poder confiar en esas palabras de ese acuerdo y que se pase de ese papel a la realidad que no dejemos pasar el tiempo

y acordar un modelo consensuado con la parte sindical de contratación y de acceso que solucione el problema estructural que he mencionado

egonkortasuna hobetzeko en definitiva un sistema educativo público de calidad pasa por una mayor estabilidad presupuestaria por una mayor planificación de la gestión

del tema del profesorado la alta interinidad tiene como consecuencia la rotación del profesorado en los centros lo que supone como sabéis como sabe el departamento

la incapacidad de planificación de los centros escolares y una reducción por tanto de la calidad de nuestra enseñanza la de todos y todas la enseñanza pública una mayor estabilidad laboral del profesorado repercutirá por tanto en la calidad de la enseñanza por tanto también en la calidad de vida en euskadi porque no se puede tolerar esa incertidumbre vital para centenares o miles mejor dicho de trabajadores y trabajadoras en euskadi porque es verdad que

que la está preparando porque sabemos que aunque no soluciona el problema de la interinidad porque lo que hace es

sabemos que es importante que salga adelante pero no por ello vamos a avalar la mala gestión de la convocatoria de esta ope ni la mala gestión de los últimos

en esta proposición por lo que he explicado hasta ahora

y lo vuelvo a decir que esta alta tasa de interinidad es fruto de muchos años de falta de planificación en el departamento de educación del gobierno vasco porque este problema

cuanto antes para que estos debates no se tengan que hacer dentro de cuatro o de ocho años eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna

nos presentamos aquí para decir que nuestro grupo presentó una enmienda a la totalidad a lo que había planteado el grupo proponente y que

hemos conseguido llegar a una iniciativa consensuada en esa iniciativa consensuada o en

se han incorporado varias cosas que nuestro grupo pedía por supuesto alguna que era lógica como el hecho en la igualdad del mérito la capacidad etcétera pero que apareciera expresamente

en esta convocatoria se nos dirá que somos

incluso pesados en nuestra persistencia pero permítanme que les den

de por qué es esta nuestra postura el consejo de europa para el año dos mil veinte pide que el setenta y cinco por ciento de los jóvenes mayores de quince años sean autónomos en inglés sean capaces de vivir en inglés y en estos momentos

en el resto de europa andan por un porcentaje del cuarenta y dos por ciento

en el resto de españa están en el veintisiete por ciento y respecto de euskadi no tenemos datos porque el informe del consejo escolar no los detalla sencillamente dice que hay grandes carencias en esto déjenme darle algunos datos más

en primaria solo tenemos por detrás en la introducción del inglés en la enseñanza a las ciudades de ceuta y melilla

y en secundaria en la pública estamos hablando tenemos por delante a castilla león a madrid a aragón a castilla la mancha

a canarias y a navarra esa es nuestra postura esa es nuestra posición en la introducción del inglés si analizamos las concertadas mejoramos porque estamos en el cuarto puesto

para la escuela pública entonces claro

que estamos obsesionados pero vamos a ver el escenario de los vascos siempre

ha sido el mundo nuestro escenario no es una diagonal que va desde

y termina el triángulo en irun no nuestro escenario es el mundo siempre lo ha sido

déjenme darles unos ejemplos de lo importante que es hemos tenido contacto con el mundo de la fp la fp si bien se ha quitado sus plazas

la fp está muy preocupada porque nos lo explicaban gráficamente el ingeniero diseña una máquina pero el que desmonta la construye luego la desmonta la lleva a polonia la vuelve a construir explica cómo se pone en marcha atiende al teléfono cuando algo no va bien vuelve a polonia a arreglarla es alguien es un técnico superior de fp y ese técnico superior de fp todo ese trabajo lo tiene que hacer en la lingua franca que es en inglés y si nuestro escenario es el mundo lo necesitamos afortunadamente una de nuestra dos lenguas que es el castellano nos permite tener relación pues creo que son trescientos millónes o una cosa así de seres humanos en el planeta

por eso nosotros insistimos vamos a ver nos ha resultado un poco difícil

transaccionar esta enmienda y por qué nos ha resultado difícil porque creemos que es una enmienda que está llena de buena voluntad pero es que nos parece que va a ser muy

y por qué va a ser muy difícil llevarla a cabo porque vamos a pedir profesores que tengan un nivel de euskera alto el que pedimos a todos pero además que tengan un nivel de euskera suficiente para dar las asignaturas en inglés para podernos lanzar al mundo y nos tememos que no lo va a ver entonces señores

en esta cámara sí un sacrilegio porque yo creo que de estas cosas es como algo intocable

yo les planteo que para conseguir esos profesores que son capaces de dar las asignaturas en inglés rebajemos algo el nivel de euskera que les pedimos y luego

a la pira nos falta la pira ahora salgan y echen la culpa a rajoy porque yo les aseguro que desde he llegado a este parlamento oigo más hablar de rajoy

bueno pero por qué lo hacemos pero por qué lo hacemos creemos que desde luego ese profesorado tiene que dar

un nivel adecuado de euskera pero creemos que lo vamos a tener que formar saben por qué porque muchas veces nosotros décimos

y eso es verdad pero cuando uno tiene un doble patrimonio pongamos cuando uno tiene dos viviendas una aquí y otra de vacaciones tiene que arreglar dos fachadas

tiene que cambiar dos cocinas es decir ser ricos y tener un doble patrimonio y en este caso un doble patrimonio lingüístico exige

es esa que por favor pidan un nivel de euskera

para mantener una conversación pero que facilite que más personas que son capaces de dar sus clases en inglés

y luego a esas personas formémoslas en que den el nivel que pedimos de euskera

horrela esango didazuela eta lo acepto como decía ayer pues estamos acostumbrados a ser los malos de la película

es la razón si racionalmente queremos preparar a nuestros jóvenes y les acabo de dar los datos se los voy a recordar en la pública en la pública en euskadi solamente están en experiencias que tampoco es

bilingües el veintidós por ciento y el resto de españa en la pública

entonces si racionalmente queremos abordar esto si verdaderamente el escenario de los vascos ha sido siempre el mundo si no nos queremos encerrar en una

de ciento veinte kilómetros para un lado y ciento veinte kilómetros para otro porque no hay más no da para más la comunidad autónoma vasca por favor pongamos

entonces lo último que les voy a decir yo esa es la primera razón por la que nos ha sido difícil llegar a consensuar y la segunda y siento hacer este reproche es porque en el tiempo que llevo en este parlamento y según me han comentado mis compañeros también yo estoy apreciando que el gobierno se deja llevar por una especie de autocomplacencia todo está bien todo está maravilloso todo marcha y yo no sé si es autocomplacencia o es autodefensa pero en cualquiera de los dos casos es la sensación que proyecta entonces vamos a ver la autocomplacencia es

para la paralización y la paralización es el estadio en que todos los demás nos pasan le voy a poner un ejemplo rápidamente hablando con el consejero

de castilla león que por cierto tiene un gran afecto un gran cariño a nuestra consejera y habla con gran simpatía de ella

calla calla que yo estoy preocupadísimo porque primero la gente a lo mejor se cree

y luego además antes íbamos los primeros en matemáticas

ya estamos preparando planes de refuerzos para matemáticas esa es la actitud

ver lo que nos falta ver lo que no tenemos y no autocomplacernos en lo que hemos conseguido que ha sido mucho pero la autocomplacencia nos paralizará y la paralización hará que nos pasen

aún así y todo queremos dar un voto de confianza al gobierno le vamos a apoyar pero sí que queremos anunciar que vamos a ser muy persistentes muy constantes y muy pesados si hace falta en el seguimiento de este tema

gracias presidenta yo le quiero agradecer a la señora bengoechea el apoyo aunque no me ha quedado muy claro si le apoya un trozo o una parte

bienvenido sea el hecho que ustedes han firmado un texto de una enmienda

vamos a darlo por bueno y quiero agradecer también al representante de elkarrekin podemos que ha hecho una aportación constructiva al debate que yo le agradezco

muchísimo nos ha sorprendido mucho viniendo como viene de una formación que se dice de izquierdas

porque proponer eso y retrasar a la vez la convocatoria de plazas para este año

otra cosa es que a ustedes les parezca insuficiente a nosotros también también se lo parece a los sindicatos en eso no tenemos ningún problema en reconocerlo

de cubrir interinidades cuando hay tantos miles que van a ir dejando sus puestos por jubilación en los próximos años

y abrirles la puerta a la calidad en su empleo es insuficiente

la oportunidad de que estas personas puedan hacerlo cuando ya se están preparando como usted sabe perfectamente por lo tanto tendría que explicarles usted porque no quiere que puedan concurrir

no acabamos de ver de verdad ninguna razón para ese retraso que se solicita

se nos diga que el próximo año se haga otra convocatoria y con más plazas ya las va a haber señora ubera pero si ya las va a haber

y además que para lo que queda de legislatura que es lo que venía a decir el representante de podemos se planifiquen convocatorias anuales si realmente queremos cubrir al menos la tasa de reposición por las jubilaciones con más plazas sí

también con diálogo social por supuesto a través de los mecanismos establecidos para ello la mesa sectorial con todas las mejoras que se quieran establecer en la misma

con distintas matices en este caso los socialistas tomamos nota y pedimos que se tengan en cuenta esas opiniones para la planificación prevista en adelante porque no todos los sindicatos han dicho lo mismo usted hablaba que solamente de lo que usted llama la mayoría sindical pero hay más vida en el mundo sindical

y no han dicho lo mismo unos que otros los primeros han dicho ugt y comisiones que les parecía insuficiente criterio que nosotros compartimos y los demás han dicho otras cosas y yo entiendo que usted quiera venir aquí a hacer de representante y poner voz

pero en fin usted debiera de hablar también como representante parlamentaria de un partido político que también tienen que velar por los intereses generales de la ciudadanía

parciales en este caso de dos sindicatos en todo caso tanto en las formas como en el fondo hay que hacer un esfuerzo especial en las muy necesarias plazas en fp

ha asumido como reto fundamental de esta legislatura y que aparece reflejado en el acuerdo de gobierno y solo alguno de esos sindicatos ha pedido que no se celebre esta convocatoria el resto los otros sindicatos está colaborando actualmente con los aspirantes para prepararse lo mejor posible para las plazas

hace poco más de dos años ustedes los mismos que presentan esta iniciativa firmaron con nosotros el grupo socialista una propuesta que no logró ser aprobada ustedes y nosotros

de convocatorias de ope estaba generando bolsa de interinidad que es lo que usted denuncia ahora ustedes y nosotros pedimos una planificación para reducir esa eventualidad se acuerda verdad se acuerda y ahora que ese reto se asume como compromiso de gobierno

ahora que sus propias demandas se encauzan aunque sean de forma insuficiente

que se retrase una convocatorio pública de empleo para la educación es

porque creo que la mitad del mundo educativo está perplejo por su postura

los socialistas sin embargo hacemos en el gobierno lo mismo que reclamamos en la oposición en aquel caso con ustedes lo que hicimos también por cierto cuando gobernábamos con anterioridad

con las arcas públicas bastante mermadas la entonces consejera de educación cumplió con el compromiso adquirido con los sindicatos el recién nacido gobierno de rajoy adelantó las limitaciones establecidas para estas convocatorias y el gobierno socialista entonces en euskadi aprovechó el último resquicio que tenía

que les diera estabilidad a ellas y también por supuesto a los proyectos educativos en los centros escolares y por ende la calidad educativa

que merecen los niños y niñas vascas por cierto un proyecto de estabilidad al que le acompañó otra ope en este caso en sanidad de dos mil seiscientos plazas

estabilizadas en esa época y ahora necesitamos más por supuesto y somos conscientes de que eso hace falta en todas las áreas de la administración

va a haber un montón de jubilaciones porque la administración vasca se puso en marcha hace ya dos décadas y simplemente

con urgencia un relevo generacional que es imprescindible una parte importantísima de ese personal se incorporó hace ya mucho tiempo

en gran medida solo eso solamente ese dato habría merecido que el gobierno de españa no hubiera sido

con las tasas de reposición y tan limitador en la posibilidad de renovar las plantillas pero ya sabemos que no ha sido un gobierno

con otros sitios y con otros gobiernos como este ahora sin embargo cuando se abre la posibilidad y cuando se da el paso que habíamos reclamado ustedes y nosotros

de aquella propuesta y de aquella necesidad nosotros solamente vamos a decir lo mismo que veníamos diciendo apostamos por mantener la convocatoria de oferta pública de empleo con carácter anual no solo para este año queremos mantener la ope prevista para todo este año queremos planificar la estabilidad de plantilla y el relevo generacional

y buscando por supuesto el acuerdo con los representantes de los trabajadores

sin perder de vista lo que a nosotros nos parece fundamental en este debate que es mantener una apuesta inequívoca por la educación pública de calidad que garantice la igualdad y la excelencia que posibilite que los niños adquieran competencias adquieran conocimientos

en valores de eso hemos hablado también en la iniciativa de esta mañana

y para todo eso para conseguir ese objetivo necesitamos profesionales profesionales formados convencidos y comprometidos y para eso necesitamos que esos profesionales

y con dignidad y esperamos que se puedan incorporar esos ochocientos dieciocho nuevos profesionales a la educación pública eskerrik asko pastor jauna

en el curso dos mil quince dos mil dieciséis se llevó a cabo con éxito una oferta pública de empleo con doscientos setenta y cinco plazas el máximo

tal y como previamente el gobierno anunció se llevó a cabo una oferta pública de empleo

nuevamente el máximo que la legislación vigente permitió que fue el del cien por ciento de las bajas netas de empleados y empleadas docentes fijas

en primera instancia se planteó una ope de ochocientos dieciocho plazas

con agentes sociales con los centros con sus responsables resultado de esas negociaciones va a salir una convocatoria

ya se está trabajando con distintos escenarios porque es compromiso del gobierno para esta legislatura mantener la convocatoria de empleo anual en educación

bat eskaini nahi diegu en la propuesta que les hemos presentado consensuada con el grupo socialista y el grupo popular

incluimos la intención de avanzar en otro de los compromisos adquiridos como es el de la extensión de los proyectos lingüísticos plurilingües al conjunto de los centros de euskadi en este caso concreto la extensión de la formación en inglés sin complejos y sin miedos como he dicho

que podrán hacerse cargo de ese reto con calidad hori da aurkeztu dizuegun proposamena beste neurri batzuk bideratu daitezela

galtzaile bestetik señor pastor

y todas tenemos el mismo tiempo para hablar que son diez minutos en el primer turno y cinco minutos en el segundo turno bueno hoy como somos el grupo proponente

quince minutos pero aparte de hablar leemos y aparte de leer intentamos estar con los agentes de la comunidad

bera esaten dute usted nos dice

que velar por los intereses de la mayoría sindical es parcial y velar por los intereses de la minoría qué es velar por el interés general

con la interlocución qué interlocución si no ha habido ninguna no ha habido ninguna

siempre a través de los cauces legalmente previstos en el decreto de relaciones laborales y sois los primeros que no cumplís la ley pero eso sí luego en el segundo punto aurreko puntuari kontraesanean erortzen zarete

negociación porque lo que se traslada es mantener la convocatoria de oferta pública de empleo dos mil diecisiete

izanda coincido en el asunto que decía de la autocomplacencia que vemos en el gobierno por eso

anteriores por eso desconfiábamos también en lo que vaya a pasar más adelante y si tenemos que rectificar y decir oye mira se ha hecho bien yo soy el primero que lo diré

esa falta de planificación creo que es también fruto de esa autocomplacencia de que aquí las cosas van bien o de esa imagen de que aquí las cosas van bien

y esto viene fruto de la gestión de muchos años de los últimos años de los gobiernos que han gobernado este país he mencionado al gobierno de españa pero es que claro que lo mencionamos porque es una pesadilla será democrática estará acotado pero es una pesadilla para este país y para la clase trabajadora sufrir ese gobierno y

la propuesta como nos propusieron y el diálogo ha estado ahí en esto sí que lo ha habido es que habla de continuar la interlocución y preguntamos qué interlocución porque lo que estoy hablando es que ha habido información

social de informaciones sin posibilidad de llegar a acuerdos es verdad que ha habido aportaciones pero no nos parece serio esa forma de interlocutar

por eso decía que no podíamos firmarlo y porque todavía no podemos tener esa confianza que nos pedían para la convocatoria de dos mil dieciocho y espero como decía acabar confiando espero

hacerlo porque los sindicatos los sindicatos también en el ámbito de la educación pública son un colectivo que forma parte fundamental no solo para relaciones laborales lo decía también para definición de las políticas públicas porque una democracia avanzada como la que presumimos que tenemos aquí

más democráticas más transparentes en las que la parte sindical sea parte activa

de la definición de esas políticas si se decía ahora es que esta ope

la han aceptado es verdad que evidentemente están haciendo formación para que la gente

de una mayor legitimación y una mayor participación y que el gobierno se tome en serio la participación de los sindicatos por tanto reitero la abstención de nuestro grupo en este punto porque hasta ahora no se han hecho así las cosas necesitamos más elementos para poder llegar a confiar en que la ope del año que viene y en la planificación vaya a ser y en aquel momento también presentaremos nuestras alternativas a las mismas que desde luego pasará por una interlocución mucho más clara y mucho más directa tanto con la parte sindical como también con la otra mención que se me había olvidado hacer que es con ehige que son la asociación de padres y madres de la escuela pública vasca que también

bueno señora sagardui me alegro de ver su seguridad

que verdaderamente tengamos capacidad de poder proporcionar ese profesorado

a nuestros alumnos y a nuestro sector de la enseñanza o sea que me alegro de su seguridad seguimos dudando porque tenemos confianza en ustedes hemos firmado la transaccional seguimos dudando pero es absurdo discutir sobre futuribles lo habremos de ver

y respecto de las otras intervenciones pues bueno ustedes creen que yo he elegido la palabra sacrilegio así por hacer

se puede hablar y si uno habla en un mundo que necesita

si las cosas no dan resultado por lo demás

muy vigilantes y ya lo último que quería decir

tiene el aval de nueve millónes de votos y también

es nuestro gobierno yo no creo que ser una pesadilla es empezar a presentar unos resultados económicos muy muy esperanzadores que en la disminución del paro por ejemplo son superiores a lo que tenemos aquí

pero aquí el nombre del señor rajoy se oye cinco veces por cada vez que se oye el nombre del señor

es que no lo puedo entender y no sé pues quizás podamos empezar a hablar de zapatero también esto va a ser divertidísimo en fin

ojalá lo que usted planea
se cumpla eskerrik asko de bengoechea

creo que tenemos más coincidencias en muchas ocasiones que discrepancias coincidimos en que el departamento de educación tiene un amplio margen de mejora

con el departamento de educación y lo vamos a seguir siendo dentro del gobierno coincidimos con usted en que hay

en que hay que cubrir la tasa de reposición en que hay que hacer convocatorias anuales de plazas en todo eso coincidimos ahora bien después de todo ese análisis compartido yo no llego a la conclusión y no entiendo como ustedes llegan de que la solución de todo eso de con carácter inmediato es no convocarla la ope no lo entiendo o retrasarla

pero no lo entiendo yo y no lo entiende la mayoría de la opinión pública y muchos profesores

del mundo educativo créanme usted que se lo digo en serio yo no le estoy diciendo que escuche a la mayoría sindical

digo que todos los sindicatos han tenido una coincidencia fundamental que la ope es insuficiente yo también se lo he dicho que lo reconozco

después hay unos que yo creo que es más razonable y yo defiendo ese criterio que dicen que a pesar de ser insuficiente hay que convocarla y a la vez

y a la vez hay que fijar el compromiso de convocatorias anuales porque solamente en estos tres últimos años por ejemplo usted tendrá el dato porque ha sido

se ha jubilado en esta comunidad mil novecientos doce profesionales de la educación no universitaria

de las jubilaciones que se han producido en estos tres años tiene margen de mejora

se puede mejorar la interlocución con los sindicatos pues también pues también no le quepa ninguna duda pero todo eso no puede ser obstáculo para llegar a una conclusión que nadie más que ustedes como ha podido ver en esta cámara comparten la solución no es

las solución es poner en marcha inmediatamente las previsiones y la planificación necesaria al menos en esta legislatura

de interinidades que se dan en la educación pública vasca y la solución está por supuesto

decidida por la educación pública ya sabemos que el sistema educativo vasco tiene la educación pública la concertada las ikastolas

de forma fundamental también por la enseñanza pública si por algo nos hemos distinguido los socialistas en este gobierno y en los anteriores es por nuestro compromiso con la educación

fernando buesa y la propia isabel celaá no creo que nadie pueda dudar del compromiso de los socialistas con la educación como eje fundamental

yo no dudo de su compromiso con la educación no duden ustedes del nuestro eskerrik asko

señor pastor lamento decirle que eh bildu no coincide en la necesidad de que tengamos opes anuales

no lo ha dicho no ha dicho eso ha dicho que no coincidía en eso que quería otro sistema hay una cosa en la que todos y todas estamos de acuerdo y es

que es necesario reducir la interinidad para que el profesorado pueda implicarse con motivación en los proyectos educativos de sus centros

y para ello las ofertas públicas de empleo son la principal medida prevista en la administración de las principales y también

puedan plantearse proyectos de vida gracias al acceso a un empleo estable y de calidad pero en esos procesos participan personas personas a las que tenemos la responsabilidad de ofrecer convocatorias que cuenten con garantías para celebrarse

en la convocatoria ese no convocar ope dos mil diecisiete

de esa demora el gobierno va a mantener el compromiso de su programa el compromiso de generar empleo de calidad y va a convocar esta ope y de forma inmediata

convocatoria negociar no significa que uno siempre tenga la razón sino negociar señora ubera porque el proceso de negociación ese que algunos y algunas siempre se realiza a través de los órganos previstos al respecto

de adaptación para poder culminar en una oferta lo más consensuada posible lo más por eso no se puede demorar más

legebiltzarkideok para elkarrekin podemos y para mí en particular como mujer es un auténtico orgullo traer una iniciativa que a pesar de parecer sencilla tiene una importante carga de profundidad en una cuestión que afecta

pero que a nosotras las mujeres nos afecta de lleno en nuestras vidas para elkarrekin podemos avanzar hacia la igualdad de mujeres y hombres es un objetivo prioritario de trabajo

porque entendemos que es condición absolutamente imprescindible para que podamos hablar de transformación de democracia y de justicia social venimos trabajando y vamos a seguir haciéndolo desde el enfoque académico y político que nos brindan los feminismos en plural porque las mujeres somos diversas y eso también se refleja

en este sentido nos hacemos eco de la larga historia de reivindicaciones reflexiones y propuestas de las organizaciones feministas en euskadi reconocemos valoramos y celebramos

pero ojo las mujeres y feministas los hombres comprometidos y que nos acompañan en esta tarea

a las nuevas generaciones que aún queda mucho por hacer que el patriarcado está impregnado en el adn de nuestra sociedad y de nuestra cultura que van de la mano y se retroalimentan

es cambiante y con ella cambian las expresiones de desigualdad que van adaptando nuevas formas mutan y surgen otros interrogantes y desafíos por eso

sobre sus vidas cotidianas sobre sus oportunidades de acceso a los derechos y sobre todo sobre

tomando el refrán popular del dicho al hecho hay un trecho

los derechos que tenemos recogidos en las normas que promulgamos desde este parlamento esto es lo que técnicamente se llama hacer

previa de impacto de género por derechos humanos por justicia social porque así lo establecen la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer la normativa europea y nuestra ley de igualdad de mujeres y hombres

sin embargo hoy no nos vamos a detener en este punto porque nos consta que desde emakunde se viene trabajando en esta línea y nos interesa profundizar en este tema más adelante y de forma particular

las causas y consecuencias de las desigualdades de mujeres

profundamente arraigadas en nuestra sociedad y como ya hemos mencionado antes cambiantes

machistas y al mismo tiempo las violencias tienen por cometido reproducir las desigualdades la violencia contra una mujer es una advertencia

para las jóvenes que deciden salir a bailar un sábado por la noche para aquellas que disfrutan de las fiestas populares para las que no quieren continuar con su pareja masculina

ejercer nuestros derechos y libertades puede tener graves consecuencias las violencias machistas son múltiples se ejercen en todos los niveles socioeconómicos y culturales en todos los espacios que transitamos y habitamos en nuestra vida cotidiana

en nuestras casas en las calles en la educación en la salud en el mercado laboral en la política en los medios

en los espacios de participación social es decir

existe consenso en torno a la necesaria revisión de la legislación en materia de violencia para ello tenemos que disponer de todos los elementos posibles

en un contexto de crisis económica para repensar con responsabilidad la normativa en materia de violencias tenemos la certeza de que necesitamos conocer con más detalles algunos aspectos del impacto diferenciado que la situación económica tiene sobre la vida cotidiana de las mujeres

en europa las mujeres son el sesenta por ciento del grupo de quienes trabajan y peor cobran según la oit la brecha salarial entre mujeres y hombres aumenta gradualmente en la medida que aumenta la escala salarial en euskadi

emakunde en uno de sus estudios indica que las mujeres son más del ochenta por ciento de las personas en riesgo de pobreza y exclusión social en octubre de dos mil seis emakunde presentó datos sobre exclusión residencial grave

estas modalidades incluyen situaciones como vivir bajo amenaza desahucio

intercambiando trabajo de cuidados por alojamiento o bajo amenaza de violencia por parte de la pareja o de la familia en el mismo estudio se afirma

las mujeres presentan mayores tasas de desempleo y peores condiciones de trabajos que los hombres

el papel subsidiario del empleo y el salario femenino dentro de la estructura económica del hogar

la menor presencia en puestos de responsabilidad la mayor participación en la

a la vista de estos y otros datos traemos una propuesta para poner la lupa y profundizar a través de un estudio la incidencia que tienen la falta de autonomía económica y la precariedad laboral que sufren las mujeres en las violencias machistas

notables trazos de verdad para iluminar algunos factores que inciden en estas violencias

y esta ley debe ser el resultado del trabajo conjunto con el movimiento feminista sindicatos empresa privada

y también será un aporte importante para poner en marcha medidas que promuevan la autonomía económica de las mujeres a través de la inserción socio laboral y otros medios

de las mujeres que han transitado por situaciones de violencia machista en el ámbito doméstico o en el ámbito del empleo

y o política que se implemente para la erradicación de las violencias machistas es necesariamente formulada desde una determinada interpretación social del problema

que hemos elegido no por casualidad para esta proposición hablamos de autonomía económica porque entendemos que la inserción en el mercado laboral debería ser solo una de las vías para que las mujeres puedan tomar decisiones sobre su vida de una forma

en este sentido defendemos la garantía de ingresos como derecho desvinculado del empleo los servicios sociales

esto es que puedan cobrar las personas individualmente en lugar de unidades de convivencia sería una medida que podría contribuir a no fomentar la dependencia económica de las mujeres o de las personas y o dependientes el apoyo familiar se convierte en una condena que impide su emancipación y las condena a la dependencia otro concepto es el de las violencias machistas

en todos los espacios que transitamos y habitamos cuando se denomina maltrato doméstico o violencia de género en singular

se impone la violencia física sobre todas las otras formas de violencia

se impone la imagen de la violencia ejercida por la pareja o ex pareja

nos remite a un fenómeno que se limita a un ámbito privado y por lo tanto al margen de la acción pública y social sobre el concepto de género

para el análisis de las desigualdades muy potente siempre y cuando sea utilizada

sin embargo hemos visto cómo en los últimos años se ha propagado

también décimos violencias machistas porque es el término consensuado en las últimas jornadas feministas y lo usamos porque en dos palabras es capaz de visibilizar también las causas de esta violencia mientras que las otras

y pueden dar lugar a confusión en la comprensión y el alcance de esta vulneración de los derechos humanos

hoy hemos logrado consensuar el contenido de esta iniciativa con el grupo parlamentario de eh bildu y confío que en esta cámara logremos el apoyo necesario para impulsar una iniciativa política

que no se esconden tecnicismos ni el lenguaje vacío para hacer frente a la desigualdad

particularmente en el ámbito social y económico eskerrik asko eskerrik asko arana

agertzen delako una iniciativa importante a nuestro entender para debatir hoy en este pleno

sufren las mujeres de la brecha salarial hay numerosos estudios la señora arana ha citado estudios de emakunde podríamos citar numerosos estudios que hacen referencia a esta cuestión y que además cifra la brecha salarial en un veinticuatro por ciento la diferencia de salario

y mujeres y las diferencias también que hay en el ámbito laboral otra de las cuestiones que nos permite abordar esta iniciativa es la situación de las mujeres víctimas de la violencia de género

pretende abordar la incidencia que tiene la precariedad laboral y la situación de pobreza de las mujeres en las víctimas violencia de género pero sí que tengo que decir que nosotros y viendo ya el recorrido

creemos que hay que hacer más actuaciones y también legislar más acciones concretas en relación a combatir la lacra de la violencia de género que creo que es una cuestión compartida digo que ya también tenemos un recorrido en esta cámara cuando

dos o tres legislaturas tres legislaturas concretamente tuvimos ocasión de constituir una ponencia para hablar de la violencia que sufren las mujeres y medidas a arbitrar un conjunto de medidas en todos los ámbitos en los que además tiene actuación y competencia el gobierno vasco quiero además resaltar que en esa ponencia el acuerdo fue posible entre todos los grupos y por lo tanto esas

por unanimidad de todos los grupos por eso nosotros consideramos necesario y viendo la oportunidad de esta iniciativa que se concretaran

deberes específicos al gobierno vasco como son la revisión de un proyecto de ley

creo que aquí además hubo una apelación directa a este compromiso por parte del lehendakari en su discurso de investidura

oportunas abordar en esta iniciativa es poner

por el partido nacionalista vasco y el partido socialista en relación a la puesta en marcha de programas de inserción socio laboral dirigido a las mujeres víctimas de violencia de género tampoco además

aparece recogida en el propio acuerdo de gobierno entre ambos partidos

la violencia contra las mujeres la violencia de género la violencia machista es uno de los principales objetivos para conseguir la igualdad y desde luego constituye uno de los ataques más graves a los derechos fundamentales como son la libertad la igualdad la seguridad la no discriminación y por tanto los poderes públicos y en este caso

acordado con el gobierno no pueden estar ajenos a esta realidad y tienen que seguir legislando aprobando medidas concretas es decir actuando para no parar y para poder combatir desde distintas ámbitos y desde una perspectiva integral abordar esta cuestión

protección asistenciales y también cómo no diseñar también planes personalizados a las víctimas de violencia de género y en todo esto tampoco podemos olvidar a los menores

familiar que son víctimas directas de la violencia de género en el tema de la precariedad laboral ya me he detenido la desigualdad existente de género no solo

puestos de decisión y ya me he referido anteriormente al dato de la diferencia de veinticuatro por ciento por eso y voy finalizando creemos que es

el arrancarle hoy al gobierno el poner en un texto concreto dos compromisos muy específicos en relación a la violencia de género

la inclusión en el calendario legislativo con un compromiso concreto de acelerar

a la remisión del proyecto de ley correspondiente al parlamento vasco en fechas próximas y también aquí el partido popular ha mostrado su exigencia en numerosas ocasiones y también viendo

si ustedes plantean que va a ser así porque nos lo hemos puesto

acuerdo que ustedes suscriben remita un proyecto de ley contra la violencia de género y que obviamente se haga a la mayor celeridad posible creo además que es muy importante avanzar en estas

que se ha alcanzado un pacto de estado entre el partido popular partido socialista y ciudadanos para reformar la ley integral de medidas de protección contra la violencia

una comisión de estudio para abordar también medidas especificas y avanzar en el abordaje a esta cuestión existen comunidades autónomas que también tienen leyes específicas

a la violencia de género pero no obstante creemos oportuno que este gobierno traiga como decía

nosotros estamos satisfechos con el acuerdo alcanzado porque los dos puntos que recogíamos en nuestra enmienda planteada en la iniciativa original del grupo podemos pues han sido incorporados a la enmienda de transacción

que el gobierno cumpla con los mandatos que hoy le pone los deberes que le pone hoy esta cámara besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko garrido andrea

en nombre de estos señores y señoras de euskal herria bildu llevo todo el día escuchando como se nos nombra hablándonos de señores y

llena de mujeres y estaría bien empezar a escuchar señores y señoras u otro tipo de términos

amaia pérez orozco ikerlariak dio que si hablar de estabilidad de la vida en quien hace la comida y ella misma responde sí y no por supuesto es hablar de eso pero también preguntarse por los megaproyectos

o la balanza de pagos lo que tiene de singular

peculiares con relaciones sociales y con posicionamiento especifico en esa cosa

gracias presidenta señorías en este último punto del orden del día vamos a tratar la iniciativa sobre la realización de un estudio de sobre la precariedad laboral de las mujeres y sus consecuencias mi grupo parlamentario los socialistas vascos consideramos que era más acertado el encabezamiento de la iniciativa

dentro de ella y donde se señala que el parlamento vasco inste al gobierno vasco a la realización de un estudio sobre la incidencia que tiene la precariedad laboral y la situación de la pobreza en las mujeres en la violencia machista

que es conveniente la realización de ese estudio pero no centrándolo solo en la precariedad laboral pobreza y mujeres sino que hay que extender este estudio a la incidencia la precariedad laboral y sus consecuencias

y a que sus conclusiones incorporen a los trabajos para la elaboración del programa marco de empleo y reactivación económica que incluya un plan específico

para ello es fundamental que el gobierno vasco promueva la igualdad efectiva entre hombres y mujeres

la discriminación en la relación laboral el acoso laboral o por razones de sexo la discriminación en la negociación colectiva el fomento de medidas de planes de igualdad conciliación de la vida laboral y familiar

en su primera comparecencia en la comisión de trabajo y justicia en este parlamento el treinta y uno de enero de este año

creemos que hay que enfocar esta iniciativa de una forma más amplia y sin ceñirla solo sobre una influencia sobre la violencia

vincular a la pobreza ya que se da en todos los niveles económicos

adquisitivo la violencia machista se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad y que se dirige a las mujeres por el mero hecho de serlo sea cualquiera que sea su posición

y sus hijos y que se generen los mecanismos necesarios para conseguirlo queremos avanzar hacia un modelo y atención que proteja las víctimas y no las

la formación además debe ser un elemento clave para todos los agentes que han de actuar en este campo la desigualdad económica enquista en general la violencia machista la desigualdad el desempleo la precariedad laboral y la falta de oportunidades laborales

pueden retrasar la salida de la víctima del infierno en que vive pues la retraen a la hora de dar el paso

la feminización de la pobreza podría redundar en un aumento de la violencia contra las mujeres al tiempo que las medidas de austeridad dejan a las víctimas

de mayor vulnerabilidad pero la sociedad española no es más o menos violenta por su coyuntura económica que pueda actuar como estresante social y condicionar el maltrato pero no lo genera esa es la clave y la diferencia en nuestra enmienda transaccional

ha supuesto un freno para denunciar por el miedo a no encontrar un puesto de trabajo y verse sin recursos para salir adelante por eso es importante llevar a cabo medidas que faciliten la inserción laboral de las víctimas y que se incluye dentro de nuestra enmienda transaccional

pero también puede incidir en que no se tenga en cuenta la brecha de género en los presupuestos en las tensiones en las prestaciones por desempleo en la ley de dependencia

falta tomar conciencia crítica del resultado de esta violencia con la tasa de desempleo actual se hace más necesaria la mejora de las redes que apoyan a la integridad laboral y faciliten el acceso a la vivienda

para su emancipación para que las víctimas de violencia puedan salir más fácilmente de esa situación los recortes en políticas de igualdad y contra violencia de género impiden reducir la violencia estructural que se ha visto agravada por factores como el desempleo de las mujeres la

pobreza la precariedad laboral la desprotección social los retrocesos en la educación para la igualdad y la pérdida de derechos laborales y sociales

desarrollar todas sus capacidades y tomar sus decisiones sin limitaciones impuestas por estereotipos de género las políticas de igualdad

erradicar la violencia de género garantizar la igualdad laboral y salarial favorecer la conciliación

laboral y familiar en el pleno del diecisiete de marzo del año pasado debatimos una interpelación del grupo parlamentario eh bildu en esta cámara sobre la precariedad laboral en general y ya se señalaba en esa intervención que el empleo era una de las principales preocupaciones

una tasa de desempleo de los jóvenes del cuarenta por ciento los jóvenes se mueven entre el desempleo y la precariedad laboral o se van al extranjero buscando nuevas oportunidades la lucha contra la precariedad laboral y el empleo ha de ser la máxima prioridad de los gobiernos para conseguir más empleo y empleo de calidad y está de este gobierno así como también es importante tener una buena red de cobertura social para minimizar los efectos de esa precariedad laboral es por ello

que presumiblemente hoy vamos a aprobar en esta cámara con el apoyo del grupo socialista el grupo nacionalista vasco y el grupo popular señora arana un lenguaje vacío recoge una serie de medidas concretas la única diferencia es el ámbito de realización del estudio ustedes presentaban en la enmienda inicial la petición de ese estudio

lo presentaban de una forma más pequeña más reducida

la necesidad de que se realice ese estudio y además definimos qué departamento lo va a realizar lo va a realizar el departamento de trabajo y justicia pero hace referencia a la incidencia que tiene la precariedad laboral y sus diferentes

se incorporen dentro de los trabajos que realice el programa marco de empleo y reactivación económica y por otro lado también para que se refuercen las acciones que promuevan toda la igualdad efectiva entre hombres y mujeres desde el gobierno también

incluya la elaboración de la ley de víctimas de violencia contra las mujeres con el compromiso de priorizar la tramitación previa a su remisión a este parlamento la inclusión de esta ley

como bien ha dicho la señora garrido en el acuerdo de gobierno firmado entre el grupo nacionalista vasco y el grupo socialista vasco y en este punto tres se plasma ese compromiso y también en el punto cuatro se hace referencia a que

dirigidas a las víctimas de violencia de género que permitan a las mismas iniciar una vida de violencia que también es señalado que es de vital importancia para que puedan ganar yo creo que es una iniciativa que recoge perfectamente todo lo que recogía la propuesta inicial del grupo

y que también coincide en gran parte con la planteada por el grupo

a que de no ser aprobada como es presumible su enmienda transaccional se sumen a la nuestra y salga con el voto
unánime de todos los partidos nada más y muchas gracias eskerrik asko

recoge elkarrekin podemos en la justificación de la proposición no de ley planteada

está directamente relacionada con la precariedad laboral y con la situación de pobreza que viven las mujeres sin negar que efectivamente pudiera tener una incidencia importante sobre esta no me gustaría dejar pasar la oportunidad de manifestar que la violencia

ligada en este caso es a la relación de desigualdad

ahí radica su origen y causa su efecto desgraciadamente en las mujeres en situación de pobreza como en las mujeres en situación económica media o alta orain arteko parte hartze ezberdinetatik

konpromisoa efektu zuzena izango duena este empleo marco contendrá un plan específico de empleo que incluirá entre otras medidas a favor de la plena incorporación de la mujer en la actividad

la inserción laboral a través de planes locales y comarcales de empleo la formación para el empleo el emprendimiento el apoyo a las pymes y a las personas autónomas

especialmente intensivos en creación de empleo y es así como nuestro grupo entendía el espíritu de la proposición no de ley planteada por elkarrekin podemos una oportunidad como decía de dar un paso más allá de diagnósticos y estudios que serán necesarios para elaborar una futura ley de violencia pero este estudio junto con otros muchísimos más tal y como decía en euskara estudios en relación con los diferentes

que pueden tener su afecto y que dote de contenido a esa futura ley así como he dicho también en euskara aportaciones de instituciones agentes

incluso relativas a la forma que la ley debería aportar tema por cierto que tendremos ocasión de debatir también creo que dentro de bien poquito ya que eh bildu también presentó

donde la cuestión de elaborar una ley o no pues también se pondrá encima de la mesa y más adelante se analizará y posteriormente se debatirá cómo deberá ser redactada esa ley contenido forma

en base a los diferentes aspectos que serán necesarios en ese menester

otros también serán necesarios como ya he dicho pero no creo que lo correcto es que lo vayamos estableciendo a golpe de proposición

este proceso tendrá su tiempo y su lugar y no obstante atendiendo a que

hemos planteado una propuesta de transacción que entendemos será más completa y satisfacía tanto las peticiones de la proposición como la del resto de grupos enmendantes redactando un texto pues mucho más completo donde instábamos al departamento de trabajo y justicia como ya ha comentado la señora sánchez a que elaborara un informe sobre la incidencia que tiene la precariedad laboral y su diferente incidencia

tal y como efectivamente la consejera san josé manifestó en sede parlamentaria no me voy a extender más en este tema gure erdibideko

no vamos a votar en contra pero creemos que se escapan del debate que traíamos a esta cámara

abarca poco aprieta y a veces ir a lo concreto y a lo pequeño pues nos da datos para poder luego hablar a lo grande señora arrizabalaga efectivamente como bien ha dicho las violencias machistas son múltiples y afectan a todos los estatus sociales y económicos de eso no tenemos ninguna duda y creo que en mí discurso ha quedado claro

y además creemos que esas pequeñas muestras hay que traerlas al debate y hay que tenerlas en cuenta a la hora de hacer la nueva ley de violencias machistas

muchas veces han propuesto cuatro puntos yo hablando del primer punto pues le digo que la precariedad laboral y la diferencia

e incidencia entre hombres y mujeres pues realmente tendremos que esto que propone en realidad debería ser

creemos que deberían de estar haciéndolo ya por eso no lo creemos importante incluir damos por hecho que lo están haciendo porque

haciendo referencia al punto dos entendemos que esto es algo que el gobierno vasco también debería estar haciendo y no creo dada la importancia de este asunto que debamos recordárselo

sinceramente damos por hecho que el gobierno vasco va a continuar cumpliendo con su responsabilidad de promover la igualdad efectiva entre hombres y mujeres

continúe cumpliendo con sus obligaciones en el punto tres seguimos hablando de una ley de víctimas de la violencia contra las mujeres y como bien ha dicho la señora etxebarrieta

otro enfoque como puede ser violencia machistas y no víctimas

y en cuanto al punto cuatro pues decirles que como ya hemos mencionado en la intervención inicial las palabras responden a visiones sociales y políticas de los fenómenos

y la inserción laboral debería ser solo una de las vías posibles para que las mujeres puedan ser autónomas económicamente así que poner en marcha programas específicos para la inserción socio laboral

en las que se ve a las mujeres como personas pasibles o débiles señorías del partido popular pnv y pse es una pena que quieran seguir con una enmienda que poco tiene que ver con lo que comentamos se

lejos de lo que planteábamos aquí y que quieran llevar este debate a su terreno para hacerse una bonita foto mostrando lo buenos que son y reforzando lo que ya deberían estar haciendo

creemos que hay que ir más lejos queremos poner el debate en las violencias machistas en el centro

porque tenemos trabajos precarios porque nos ningunean y nos invisibilizan porque sufrimos muchas y diversas

porque creemos que es necesario empezar a hablar de cómo articular la ley de violencias machistas de quienes deben intervenir en la realización de esta y qué tenemos que tener en cuenta

por llegar a acuerdos poner esta cámara un debate valiente y necesario y empezar a construir los mimbres para conseguir una ley de violencias machistas valiente justa y necesaria eskerrik asko

tiene que mirar con otros ojos este acuerdo porque es un buen acuerdo

en el ámbito entre hombres y mujeres hablar de reforzar acciones en el ámbito de la igualdad

hablar en un tercer punto que es una de las peticiones de este grupo en relación a que el gobierno incorpore en el calendario legislativo el proyecto de ley de atención a las víctimas de violencia de género y que finalmente se pongan en marcha

socio laboral inserción laboral yo creo que es algo importante yo creo que hoy esta cámara da un paso adelante y yo lamento pues que ustedes los grupos eh bildu y podemos no se hayan sumado finalmente a este acuerdo que es un abarca distintos ámbitos y uno fundamental que es el de la precariedad laboral de las mujeres y el otro el de las víctimas de la violencia machista que además es que le instamos y le ponemos deberes muy concretos al gobierno que esperemos que más pronto que tarde los cumpla

estaremos vigilantes y sino pues más pronto que tarde también tendrá usted una pregunta respecto a esta cuestión en este parlamento besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko garrido

si quiere beno besterik gabe

no bueno mis disculpas por haberme adelantado antes señora presidenta y señora etxebarrieta ya lo siento

desde mi escaño creo que en la defensa de la iniciativa que se ha planteado hoy aquí en el discurso hemos coincidido yo creo al escucharnos

en gran parte con lo cual yo creo que sigo pensando que la iniciativa digo que la enmienda transaccional que hoy vamos a aprobar y que hemos firmado con el grupo nacionalista vasco y con el grupo

recoge más ampliamente más cosas dentro de la elaboración de ese estudio y además define qué departamento dentro del gobierno vasco lo tiene que hacer con lo cual al ser mucho más amplio no va haber ningún problema porque es que abarca lo que ustedes proponían más más cosas que incluye esa iniciativa y recoge otra serie de deberes para el gobierno como es la elaboración y la inclusión dentro del calendario laboral de esa ley de víctimas de violencia contra la mujer

que esas cosas o el nombre de las leyes etcétera también se debaten a la hora de elaborarlas y definirlas en el último momento yo creo que

la intención o la obligación que se recoge dentro de la misma la elaboración lo que tiene que primar y no el nombre que se vaya a dar a esa ley o no y luego por otro lado también recoge algo importante que es

en relación a la inserción socio laboral que son tan importantes y son vitales

la incorporación de las víctimas de violencia de género a la sociedad para que puedan salir de la situación que están

unas medidas muy concretas importantes y que todas en su conjunto creo que son muchos más amplias que la iniciativa inicial con lo cual yo creo que no habría ningún problema para que les invito a que se sumen a la hora de votar nuestra enmienda transaccional para que

por los tres grupos que lo vamos a apoyar que es lo importante para las
víctimas de violencia de género nada más y muchas gracias eskerrik asko sánchez

andrea señora arana no me malinterprete no tenemos ningún problema con que se debatan cuestiones en relación

en esta sede por supuesto que no el tema es que

de diagnósticos informes peticiones van a ser valer a la hora de posteriormente elaborar la ley entendíamos que

momento para solicitarlas tramitarlas y demás es el momento de la tramitación de la ley no por otro motivo por eso no me malinterprete por favor que todas las veces que tengamos que

al respecto no habrá mayor problema para ello efectivamente es un tema lo suficientemente importante como para hacerlo pero yo sigo con mis reflexiones me ha hecho gracia

segunda breve intervención cuando tanto la señora arana como la señora etxebarrieta

y en nafarroa que yo sepa gobiernan ustedes gobierna eh bildu y gobernamos nosotros también entiendo que ahí no ha habido ningún problema en relación con la terminología y yo entiendo que aquí tampoco lo habrá por eso yo sigo creyendo que

eran otros motivos y por eso yo sigo creyendo que el interés que había detrás de esa proposición no de ley